neurri mota hartzeko asmoa dauka por una parte tiene previsto impulsar

de permisos en materia de conciliación de la vida personal laboral y familiar una actualización normativa que necesariamente tiene que producirse en el marco de la próxima ley de

calendario legislativo que próximamente se remitirá a la cámara y que el gobierno tiene previsto iniciar su tramitación ya en los próximos días tenemos previsto también por otra parte impulsar el teletrabajo

eficaz instrumento para el estímulo el fomento de la conciliación de la vida personal con la familiar y la laboral de las más de cien personas que han vivido esta experiencia en los últimos años en el seno del gobierno vasco el resultado acreditado es positivo y la valoración óptima tanto por parte de las

departamentos que han impulsado esta medida y en tercer lugar tenemos previsto también implementar las medidas de conciliación contempladas en el primero plan de igualdad aprobado al final de la pasada legislatura al que ha hecho usted referencia en su pregunta un plan

después de una intensa negociación con la representación sindical y un amplio acuerdo y respaldo de la representación del personal

de las previsiones contempladas en el primero plan de igualdad apuntan básicamente

de permisos que obedezca a tres objetivos fundamentales en primer lugar un sistema de permisos que esté más acorde con las exigencias de la sociedad actual

que plantea necesidades inéditas novedosas desconocidas hasta ahora y a las que hay que dar respuesta específica también por parte de las administraciones públicas el gobierno ha empezado ya a actuar en ese terreno y esta misma semana he tenido ocasión de anunciar la decisión

para ir equiparando los supuestos de gestación subrogada a los de adopción en el ámbito de la concesión de permisos por maternidad y por paternidad en segundo lugar medidas también que contribuyan a fomentar el mejor reparto el reparto más equilibrado y equitativo de las responsabilidades familiares entre los hombres y mujeres usted

aunque los permisos por el cuidado de personas

permisos que se solicitan por los empleados del gobierno vasco son

un sistema de permisos que contribuya que permita también ayudar

con tasas de natalidad que son francamente preocupantes sabemos que estos objetivos superan con mucho las competencias de atribuciones que tiene el gobierno

que si los objetivos se tienen claros la actuación debe ser coordinada por parte de los distintos responsables públicos de manera que cada uno en el ejercicio de sus competencias trabaje coordinadamente para la consecución de estos objetivos de facilitación de la conciliación de la vida personal con la privada y familiar que son creo yo compartidos ampliamente o compartidos por la sociedad y

para miles de pensionistas vascos y vascas que pienso que no puede abordarse más que desde el rigor estamos hablando del futuro de las pensiones de los ingresos

al crecimiento económico y sostenimiento del actual sistema de pensiones

defendiendo un sistema público de pensiones un sistema público de reparto y de solidaridad intergeneracional

sobre la situación del actual sistema público de pensiones sobre la seguridad y dignidad de las pensiones estamos decididos a aportar soluciones

para realizar este trabajo se requiere tiempo informes y sobre todo rigor mucho rigor como aportación para mejorar y acercar el actual sistema de pensiones a la ciudadanía vasca nos hemos planteado el objetivo de conseguir en esta legislatura

vamos a negociar en el gobierno central en los términos que se establecen en la disposición transitoria quinta del estatuto de autonomía queremos establecer los convenios oportunos que nos permitan esa gestión sin romper el carácter unitario y de reparto al principio de solidaridad del sistema de pensiones

sobre el resultado de una encuesta entre los economistas y las economistas de la comunidad autónoma

para los que han contestado y para los que lo han analizado estamos hablando de opiniones de los y las economistas vascas opiniones por cierto muy diversas según territorio edad

todas ellas desde mi punto de vista son respetables pero no suficientes para que este gobierno vasco se defina sobre la viabilidad de un sistema vasco propio de pensiones

posicionarse sobre algo tan importante a la vista del resultado de una encuesta eskerrik asko

bai ala ez es que no son cuatro personas que pasaban por ahí son cincuenta y siete por ciento de economistas vascos y vascas nos gustaría saber quién nos va a responder

de pensiones propio para euskadi no es asumible la consejera de trabajo y justicia que afirma que por su posicionamiento ideológico y político como por respeto a la legislación y a la viabilidad económica considera que no podemos asumir gestionar las pensiones la que no quiere romper la caja única la que hace referencia al informe de octavio granado o si por el contrario nos está contestando una consejera que forma parte de un gobierno que considera prioritario un sistema vasco de pensiones

a este lado hacia usted sobre quién recae esta responsabilidad y creemos que merecemos una respuesta clara porque este es un problema que no solamente afecta a los y las pensionistas de hoy pensionistas que tienen que estirar su pensión como un chicle de manera desorbitada para llegar a fin de mes en muchas ocasiones porque no solamente se hacen cargos de ellas y de ellos sino de otras unidades convivenciales

sistema sortzea delako porque las extracciones que ha hecho el ministerio de empleo y de seguridad social para equilibrar los desfases anuales han dejado la hucha de las pensiones con telarañas la mayoría de este parlamento la mayoría de la sociedad vasca considera que la gestión de las pensiones debe abordarse urgentemente porque solicitamos el traspaso del régimen económico de la seguridad social y porque queremos construir cuanto antes un sistema vasco de pensiones públicas

porque es absolutamente necesario porque la vaca ya no da para más es lo que reclama la mayoría de esta cámara está firmado lo que no sabemos muy bien es dónde
se posiciona usted eskerrik asko eskerrik asko blanco anderea erantzuteko

con algo tan delicado como es el sistema de pensiones o las pensiones de nuestros mayores como le he dicho en mi primera intervención este gobierno quiere que el actual sistema se apuntale y que se mejore y que tenga un futuro sostenible nuestra prioridad es que todos los ciudadanos y ciudadanas vascas

que les permitan satisfacer sus necesidades vitales ese es nuestro objetivo

sentido predicamos con el ejemplo y por eso tenemos establecido sistemas a través de la renta de garantía de ingresos para complementar las pensiones cuando estas no alcanzan para asegurar una vida digna usted insiste en la necesidad de crear un sistema vasco propio de pensiones por mi parte le reitero que ese no es el debate

y por ello le vuelvo a decir que vamos a reclamar la transferencia de la gestión del régimen económico de la seguridad social queda claro por tanto que defendemos un modelo que está buscando ahora la garantía de la sostenibilidad y la solidaridad puede haber otros pero nosotros apostamos

indemnizaciones a trabajadores y trabajadoras solicitudes de informes a consultoras privadas

egun on guztioi señor martínez he trasladado la pregunta que nos había anunciado a la dirección general de e i te be y le voy a facilitar tal cual los datos enviado referidos al año dos mil dieciséis son los siguientes datos de indemnizaciones pagadas a trabajadores y trabajadoras en e i te be veintinueve mil treinta y ocho euros en etb ciento trece mil seiscientos diez euros en eusko irratia doscientos nueve mil quinientos treinta y dos euros

en cuanto a minutas de abogados en e i te be sesenta y cinco mil quinientos sesenta y nueve euros en etb

y en e i te be net treinta y tres mil ochocientos ochenta euros

no constan otros gastos de consultoría eskerrik asko eskerrik asko

teníamos y que tenemos a pesar de los datos de dos mil dieciséis porque

en ese año son fruto de lo que consideramos y lo que en ese momento se consideró también como el primer ere en el sector público se me dirá que eso no fue un ere pero la realidad actual en este momento es que el veinte por ciento de la plantilla de eusko irratia fue despedida durante muchos años

de radios a una mercantilización a falsos autónomos sin ningún tipo de derechos pero sí

de convenio esto desemboco como saben en una inspección de trabajo que condenó a una multa de siete millónes de euros al ente y además a pagar tres millónes de euros anuales desde el año dos mil once una cuantía que como estas que como este medio millón de euros que

públicos una situación además que se hacía con profesionales de la casa con profesionales de cantera formados en el ente público y además con una dilatada experiencia profesional

dirección del ente decidió eliminar porque era un símbolo de esa mala gestión y de esa chapuza que se había hecho por parte

eusko irratia porque se sacaban ope de una de dos de tres plazas y se hacían contratos mercantiles para el resto de las personas para poder sanear las cuentas y una situación que provocó como saben una de los elementos que provocó también

a pesar de la reprobación de etb seguiremos preguntando sobre el tema pero no sé si el departamento es consciente de que a pesar de que

hemos hecho referencia de los despidos colectivos el proceso judicial por el desarrollo de la ope no ha finalizado y están pendientes de resolución por vía judicial

a estos trabajadores y trabajadoras despedidas en caso de que sean declarados improcedentes

los costes judiciales que tendrían que asumir en el caso de que estas personas hayan conseguido plaza tras la ope quieran reclamar sus legítimos derechos porque también recordamos en el día de hoy los múltiples juicios en el que se ha tenido que indemnizar a trabajadores de etb como fueron

tuvieron que readmitir en ese momento a veinticuatro trabajadores de eme cuatro efe que estaba en concurso acreedores además no sé si el departamento podría explicarnos que teniendo un gabinete jurídico propio y otro externo además contratado se hacen consultas a gabinetes de abogados como garrigues walker para asesorar a la directora del

sabe el coste de estas consultas que se hacen

gabinete externo y de la propia consultora y por último nos preocupaba

de establecer un porcentaje al menos del diez por ciento

andrea zurea da hitza gracias señora presidenta buenos días
egun on consejera el próximo veintidós de febrero se va a celebrar en madrid la conferencia sectorial de justicia que va a reunir al ministerio de justicia con aquellas comunidades que como la nuestra tienen competencias asumidas en materia de justicia uno de los asuntos a tratar y que a nosotros los socialistas hemos considerado y seguimos considerando muy importante es el relativo al registro civil que en los últimos tiempos ha sido objeto de diversos intentos de privatización en esa estrategia de la derecha

por eso en la legislatura pasada desde el grupo socialista lideramos en sede parlamentaria varias iniciativas de defensa de todos los servicios públicos en el caso

en defensa de un registro civil público y gratuito y he de decir que todas esas iniciativas contaron con el apoyo de todo el arco parlamentario a excepción del partido popular

estas iniciativas junto con otras obligaron al gobierno del partido popular

uno de los mayores rechazos conocidos no solo por todo el personal del registro no solo por los operadores jurídicos asociaciones y colegios profesionales sino también

el grupo parlamentario socialista vasco sigue apostando por un registro civil público y gratuito y es de interés para nosotros conocer de primera mano

le hemos formulado la pregunta cuál es la posición que va a defender su departamento respecto del registro civil en la próxima conferencia sectorial de justicia muchísimas gracias

se va a celebrar en madrid la conferencia sectorial en materia de administración de justicia que como usted sabe es el órgano de colaboración entre la administración del estado y

de provisión de medios materiales económicos y personales necesarios para el funcionamiento de la administración de justicia y en ese foro vamos a tratar

al registro civil a mí como consejera del departamento de trabajo y justicia me corresponderá defender la posición del gobierno vasco en esa reunión posición que

y consecuente vamos a defender en madrid lo que defendemos aquí y que está perfectamente en línea con lo que el parlamento aprobó en la pasada legislatura concretamente en los plenos de veinte de febrero del dos mil catorce y diecinueve de febrero de dos mil quince en

un registro civil público gratuito cercano y accesible electrónico y al servicio de la ciudadanía un registro civil público y gratuito porque sin duda los caracteres esenciales que definen a los servicios públicos gratuidad y la utilidad pública un registro civil integrado en la administración de justicia y digo esto expresamente

entender en el sentido de que sus encargados ya no serán los jueces y juezas y magistrados y magistradas

a la función jurisdiccional es decir a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado señorías esta medida implicaría a juicio de este gobierno incluir a los letrados y letradas de la administración de justicia que han de encargarse del registro civil en la transferencia de la administración de justicia

mantenimiento de todos los puestos de trabajo existentes en la actualidad respetando la actual estructura de oficinas de registro civil en cada partido judicial

porque estos son en nuestra opinión un elemento indispensable para garantizar la justicia de proximidad y finalmente un registro civil electrónico

también quiero compartir con ustedes un relato del recorrido que nos ha traído hasta aquí durante la legislatura dos mil once dos mil quince el partido popular

mediante la disposición adicional vigésima del real decreto ley ocho barra dos mil catorce este intento de privatización fue rechazado por los trabajadores y trabajadoras del registro civil por numerosísimos ayuntamientos y parlamentos autonómicos como por ejemplo este y que como he señalado antes se posicionó claramente en contra en dos ocasiones

políticos lo que finalmente y afortunadamente provocó su derogación por ello espero que cuando el próximo treinta de junio entre en vigor la ley

aspiro en definitiva que tengamos una ley del registro civil en sintonía con países de nuestro entorno

alonso jauna zurea da hitza gracias señora presidenta señor lehendakari señorías muy buenos días le pregunto hoy
por los presupuestos que va a presentar la semana que viene que aprobará el martes en el consejo de gobierno a estas alturas imagino que tiene ya más que pergeñadas las líneas generales y el camino van a tomar me parece y a nuestro grupo le parecen que son importantes

cuál es el rumbo que vamos a seguir también porque a nosotros nos parece que es buen momento para cambiar una inercia la inercia de los años anteriores en los que aunque es verdad que todavía no hemos llegado al nivel de ingresos que tuvimos antes de la crisis vemos que no es posible sujetar el incremento del gasto corriente que sufre por tanto la capacidad

de la actividad en euskadi y donde también

social que da lugar a una población eso sí con escasas posibilidades de integración laboral yo creo que hay cosas

sobre las posibilidades de las familias por tanto nos parece buen momento buena ocasión para marcar

que coincide con las declaraciones que yo le he venido escuchando y que comparto en el sentido de que la mejor política social es el empleo y por tanto la mejor política presupuestaria es la que apoya aquellos que tienen que crear ese empleo después de esta semana de ciertas

fiscal me parece también que para usted y para nosotros es ocasión

trasladar un mensaje de confianza y marcar una línea clara de futuro nosotros tenemos una responsabilidad en euskadi señor lehendakari aunque estamos en la

nos gustaría poder ejercerla y nos gustaría poder coincidir con usted en las líneas de lo que va a ser el presupuesto que presente la semana que viene eskerrik asko

señor alonso el proyecto de presupuestos que

así estimamos presentarlo a la cámara responde a las dos preocupaciones básicas que nosotros entendemos tiene la sociedad vasca uno garantizar las necesidades esenciales de las personas y dos favorecer un crecimiento sostenible que genere

y lo vamos a hacer respetando los criterios de rigor de realismo y de responsabilidad y lo vamos a hacer cumpliendo así vamos a cumplir

vamos a mantener las plantillas presupuestarias de personal de la administración general e institucional vamos a respetar las previsiones de ingresos acordadas en el consejo vasco de finanzas vamos a garantizar la prioridad de los servicios esenciales tres de cada cuatro euros tres de cada cuatro euros disponibles se orientan a gastos social

el setenta y seis por ciento del presupuesto salud educación y protección social contarán con más recursos vamos a favorecer la economía productiva vamos a favorecer el crecimiento y la creación de empleo estamos saliendo

desde marzo del año dos mil trece se crea empleo hemos comprometido un nuevo programa marco de reactivación económica y empleo que contará con una votación

y este mismo año hemos comprometido cinco millónes adicionales para programas de empleo juvenil vamos a ofrecer la ayuda para una experiencia laboral a veinte mil jóvenes en esta legislatura y vamos a incrementar en un cinco por ciento

nuestra prioridad señor alonso se corresponde con la prioridad de la sociedad vasca más y mejor empleo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

yo entiendo que nosotros debemos hacer unos presupuestos que vayan en la dirección de favorecer las posibilidades que tiene la sociedad vasca

la iniciativa privada que está denostada por alguna parte de la bancada de esta cámara la iniciativa social cuya colaboración es indispensable para garantizar

el presupuesto y yo no le voy a decir que no me gusta la música si realmente luego eso es así y por tanto recuperamos la capacidad de incentivo que tienen que tener

los presupuestos aquí en euskadi y por tanto realmente estando orientados hacia el empleo yo muchas veces lo que he visto en cambio es que cuando se hacen los presupuestos

que en pensar en lo que necesita la sociedad y si usted se compromete entonces nosotros

de la administración condiciona la presentación de las cuentas dice que van a ser realistas y yo lo espero porque cuando un presupuesto no es realista o la previsión de ingresos

por el conjunto de la opinión pública pero en definitiva lo que le quiero decir es que si usted hace unos presupuestos mirando hacia ese lado de la bancada

modelo cargado también de viejos prejuicios ideológicos

en fomentar la iniciativa privada y en dar oportunidades reales

si usted no mira a ese lado de la bancada usted no está solo tiene mayoría tiene capacidad tiene posibilidades

de consolidación y de crecimiento gracias eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

señor alonso en mi primera intervención le he apuntado por dónde van a ir las líneas maestras del proyecto de presupuestos atendiendo a las dos preocupaciones básicas insisto garantizar las necesidades

que genere oportunidades de empleo de calidad yo le agradezco señor alonso le agradezco su tono y le agradezco su disposición al acuerdo porque esto es lo que espera nuestra sociedad y creo que el inicio de esta legislatura ha de ser el inicio de la salida de la crisis de manera definitiva desde el acuerdo y en ese sentido se trata de trabajar en serio porque fuera de este parlamento efectivamente hay muchas personas que lo están pasando mal y ni quieren

euskadi es verdad tiene un índice de pobreza inferior al del estado y queremos bajarlo un veinte por ciento más

estamos a la cabeza en inversión pública en sanidad y en educación hemos habilitado recursos para compensar el copago a medicamentos o el copago de medicamentos a quienes más lo necesitan

a las personas en salud o educación pero el sistema vasco de protección social es consecuencia de un esfuerzo colectivo para garantizar una vida digna a quienes más lo necesitan

atendiendo lo que es su tono y disposición yo recojo espero que usted también haya recogido lo que es las líneas maestras por las que queramos avanzar

porque ciertamente el primer año de esta legislatura sea el primer año y definitivo de salida definitiva también de la crisis económica eskerrik asko

a la vista de quienes como yo seguíamos el asunto a través de los medios de comunicación fue sin duda satisfactoria familias evacuadas de forma segura realojadas en viviendas públicas obras de estabilización de la ladera que comienzan de inmediato reuniones interinstitucionales para coordinar las actuaciones

en particular la respuesta del gobierno vasco y la suya propia estuvo en esos momentos a la altura de las circunstancias y le felicitamos por ello las familias fueron alojadas en viviendas de alokabide

y otra para ayudar a los comercios afectados hasta ahí todo bien

hace un año desconectamos la radio apagamos la televisión y doblamos los periódicos pensando que el asunto estaba cerrado sin embargo para muchas de las familias

cuándo arreglarán las fachadas cuándo recuperarán sus recuerdos cuándo podrán dormir de nuevo en sus camas

ya le adelanto desde ahora que esta interpelación no tiene como finalidad por supuesto exigirle las responsabilidades por lo que ha sucedido porque aquí se acumulan una serie de circunstancias desgraciadas cuyas causas me referiré más tarde

la de pedirle que retome el liderazgo sobre esta cuestión que afecta a la labor de varias instituciones en su calidad de máximo representante institucional del país han venido a este pleno algunaa de esas familias afectadas a intentar reunirse con todos los grupos políticos después

preocupación porque pensamos desde elkarrekin podemos que el asunto no solamente no está encauzado sino que todo lo emprendido hace un año que estuvo bien

de euros para cubrir el coste de las obras de urgencia y emergencia que se precisan para estabilizar la ladera

y lo que es más importante ochenta y cuatro familias siguen fuera de sus casas lejos de sus recuerdos y sus vivencias

por qué le pedimos que lidere la respuesta a este problema por dos razones la primera es que el ayuntamiento de ondarroa no tiene capacidad financiera suficiente para abordar en solitario

en total dieciocho millónes de euros las obras y el ayuntamiento ha pedido un prestamo de dos millónes de euros y está sufragando los costes de los alquileres de alokabide

y se decide que se puede construir una promoción municipal de viviendas en un lugar como kamiñalde alguien tendrá que responder de la idoneidad de ese plan por el proyecto de construcción o por la correcta ejecución de las obras pero también hay una responsabilidad subsidiaria en este caso en la diputación que es quien da el visto bueno a ese plan de ordenación

año dos mil diecisiete ha destinado un presupuesto de cero euros para las obras de urgencia y esta es precisamente la segunda razón por la que le pedimos que lidere la respuesta al problema de kamiñalde porque parece que a la diputación de bizkaia

se ha puesto de perfil aun a riesgo de que las familias puedan pasar un año más fuera de sus hogares que por desgracia y dado el avance de las obras

desde elkarrekin podemos que debe ser el gobierno vasco la institución que desbloquee en primera instancia el grave problema de financiación que sufren las obras y que a posteriori sin duda

las responsabilidades patrimoniales en las que hayan incurrido bien las empresas o bien las instituciones implicadas entre las cuales entiendo que no está el propio gobierno vasco

realicemos esta interpelación acerca de las acciones que tienen previsto llevar y le invitemos a que

afirmativa a esta interpelación que le hacemos de liderar este asunto gracias eskerrik asko becerra jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria

etorkizunean arazo honetan kamiñalderen inguruko arazo horretan dentro de las competencias del gobierno hori

de uno de octubre es clara a ese respecto cuando dice que los actos administrativos son nulos de pleno derecho cuando son dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la competencia o del territorio y usted me dirá y bueno y cuando la incompetencia de los órganos no es manifiesta qué ocurre incurre también en ese caso la administración en un vicio

quiero con esto decir que efectivamente todo el ordenamiento jurídico

configura la actuación de las administraciones públicas en torno a la idea central de la competencia las administraciones están habilitadas para actuar pero para hacerlo

y si esto ocurre con el derecho administrativo en buena parte ocurre también en el ámbito del derecho penal no quiero establecer una equivalencia automática que sería absurdo establecer entre las actuaciones administrativas nulas de pleno derecho por falta de competencia y el delito de prevaricación pero nadie se le oculta que un porcentaje no desdeñable de delitos de prevaricación reconocidos por los tribunales de justicia tienen que ver

de los responsables públicos al margen de las competencias que tienen legalmente atribuidas el asunto es todavía más complicado

viciadas de incompetencia que tienen por objeto hacer efectivas transferencias económicas de fondos públicos bien sea a favor de personas físicas o jurídicas o bien sea a favor de personas entre las jurídicas públicas o privadas es igual las transferencias de fondos públicos que nacen

se pueden transferir solamente cuando exista un título jurídico que lo justifique

jurídico que lo justifique entra en juego la responsabilidad patrimonial la responsabilidad contable

malversación de fondos y demás bien a qué viene toda esta

qué es lo que el gobierno exactamente ha hecho en el asunto al que usted se refiere y qué es sobre todo lo qué puede hacer con arreglo al ordenamiento jurídico a las competencias que legalmente tiene atribuidas que es el marco en el que obligada y necesariamente se tiene que mover si no queremos provocar la inmediata activación de esos mecanismos de anulabilidad o de responsabilidad contable o penal a la que antes he hecho referencia

y no voy a insistir en ello quizá le faltaba poner énfasis un énfasis en especial en el hecho de que inmediatamente después de sucedidos los hechos al que se ha referido

para atender de manera inmediata e inaplazable a las necesidades urgentes planteadas allá una contratación que en este caso al tramitarse por la vía de emergencia es posible llevar a cabo sin promover la concurrencia sin expediente administrativo y además sin la existencia previa o la acreditación previa de una dotación

inadmisible por la legislación en el resto de los procedimientos pero en el caso de la emergencia

de la actuación vinculada a la emergencia y a los daños

esta genera está autorizada en ese momento el gobierno activa sus competencias actúa en el marco de sus competencias usted ha citado los supuestos

nada más producirse los hechos activa competencias en materia de protección civil y activa competencias en materia de servicios sociales y activa incluso también competencias en materia de comercio

para sufragar los gastos de traslado de los comercios que tenían que cambiar su negocio a otro local como consecuencia de la situación generada en la urbanización

a consecuencia de los desprendimientos pero además se adoptan otras serie de medidas para atender a las necesidades urgentes provocadas por el desalojo y el traslado de domicilio

y la tierra y hay que proveer a su necesidad inmediata y a eso atiende el gobierno activando su competencia de materia de servicios sociales y de protección civil

el realojo de las familias afectadas en viviendas localizadas en las inmediaciones

o sea en el entorno inmediato del mismo claro fuera de la competencia del gobierno

una medida una medida que tiene que ver precisamente con la contratación de emergencia abordada por el ayuntamiento para promover la estabilización de la ladera para paralizar los desprendimientos que estaban incrementando el riesgo y el peligro que

esta medida excepcional que adopta el gobierno ha adoptado recientemente además

contribuir solidariamente a sufragar unas obras que el ayuntamiento

de una excepcionalidad justificada o vinculada a la emergencia de la situación las medidas

el ayuntamiento promueve esa contratación de emergencia porque esa respuesta inmediata es absolutamente indispensable y el gobierno conjuntamente con otras instituciones

contribuye con carácter excepcional y con vinculación estrecha a la naturaleza de la emergencia a

subvenir esa necesidad de recursos que tiene el ayuntamiento para afrontar estrictamente

claro esta es una actuación que no está prevista en el reparto competencial es una actuación del gobierno vasco que en el caso del gobierno central incluso

el gobierno vasco actúa aquí claramente al margen de las competencias expresamente atribuidas

en una excepcionalidad asociada a la emergencia

yo no acabo de encontrar en qué otros títulos puede justificar su actuación y menos aún una actuación

yo estoy dispuesto a escucharle a usted si conoce otros títulos competenciales que puedan justificar la actuación del gobierno si quiere después repasamos esos títulos competenciales

pero la responsabilidad del gobierno está sobradamente cumplida con la actuación llevada a cabo en el marco de sus competencias como usted señala en su interpelación e incluso con actuaciones que

pero a través de una actuación claramente excepcional y por excepcional única asociada a la emergencia a partir de ahí pues cada institución deberá activar sus propias competencias

como muy bien ha dicho señor erkoreka evidentemente en nuestra interpelación era respecto a las competencias del gobierno y comprendemos perfectamente que

está limitada eso es evidente bien es cierto que el gobierno tiene una competencia de vivienda

en general utiliza el gobierno de forma habitual que son convenios más o menos ordinarios o extraordinarios con otras instituciones para desarrollar actuaciones en ese sentido

es cierto que el gobierno ha hecho lo que le correspondía hacer hasta ahora

pero también es cierto que usted me ha hablado con razón de que esto es una situación excepcional es decir

compran una vivienda en un sitio donde las propias instituciones les han dicho que se puede vivir y que se puede construir y por el motivo que fuera sean por razones

no se les puede decir que no hay nada que hacer al respecto tampoco se les puede entiendo yo

contra quienes hubieran tenido responsabilidad en que esas viviendas se hubieran construido ahí o hubieran construido inadecuadamente creo que es una cuestión de liderazgo institucional que no tiene nada que ver con el ámbito competencial y es el que le reclamamos al lehendakari o al gobierno o a usted mismo el dar una respuesta a esas familias no escudándose exclusivamente en la cuestión competencial ustedes

una partida de dos millónes de euros y ha sido con carácter excepcional como usted dice

diciendo que si ahora mismo por falta de financiación esas obras se paralizan existe el riesgo de que la ladera siga cayendo por lo tanto la excepcionalidad existe

en eso estoy de acuerdo con ustedes lo que digo es que se necesita un liderazgo en el país para decirle a la diputación de bizkaia que no se puede poner de perfil en este asunto

otra quisiera cumplir pero no tiene capacidad financiera y otra tiene capacidad financiera pero no quiere cumplir porque claro si la diputación de bizkaia no tiene competencias en viviendas por qué está haciendo promociones de viviendas por toda bizkaia

y si las tiene que asuma esa competencia y asuma la responsabilidad subsidiaria de haber aprobado el plan de ordenación

no les pedimos que pongan ustedes el dinero obviamente no les pedimos que lleguen a la prevaricación

que utilicen ese liderazgo que creo que están en disposición de tener para dar una respuesta a estas familias aquí no podemos escudarnos en la cuestión competencial es lo único que pretendo decirles y con eso no me gustaría tampoco que este fuera un asunto de debate político porque lo que creo es que es un problema humano de la gente entonces tenemos que darle esa respuesta

moderada porque no queremos desde elkarrekin podemos llevarnos una medalla

una determinada institución nuestra intención es que este problema humano tenga una respuesta
entiendo que esa disposición la tendrán ustedes también gracias eskerrik asko becerra jauna erkoreka jauna zurea da hitza

comparto con usted la idea de que efectivamente el problema es sobre todo humano o que nos afecta y atañe sobre todo porque es humano no y por tanto

ha respondido a esa naturaleza del problema el lehendakari estuvo desde el principio muy atento a la cuestión

de varios consejeros desde el primer momento en el momento en el que se produjeron

mostrando cercanía apoyo y respaldo de todo tipo a partir del momento en el que se define el panorama de la actuación de las instituciones yo mismo estoy personalmente con una comisión de delegada encabezada por la representación del ayuntamiento de ondarroa no y después mi equipo ha estado permanentemente formando parte de los foros de encuentro que han tenido lugar

para afrontar esta situación asumiendo las responsabilidades que nos corresponden el gobierno y el lehendakari al frente del mismo por supuesto no tiene

un liderazgo que no puede en ningún caso suplantar o sustituir lo que es el marco competencial vigente en la materia y yo antes usted me ha citado la naturaleza pública de las

perdón el impulso público del que nacieron estas viviendas y demás pero fíjese estamos hablando

no estamos hablando de una promoción del gobierno vasco sino de una promoción municipal

a través de una sociedad pública cien por ciento municipal llamada ondarroa lantzen la intervención del gobierno vasco en el proceso de planificación urbanística y de construcción de esas viviendas

repleta de viviendas privadas de muy diferente naturaleza pero impulsadas por el gobierno vasco a través de promociones del propio ejecutivo no es el caso de estas

puede operar la competencia en materia de montes pero la competencia en materia de montes

a los territorios históricos para los montes aprovechamientos servicios forestales guarda forestal suelos forestales

claro luego está el rescate financiero del ayuntamiento en el supuesto de que el ayuntamiento pueda

unas obligaciones que exceden con mucho de su capacidad financiera pero es que todo el mundo sabe también que la tutela financiera de los

en euskadi corresponde a las diputaciones forales a los territorios históricos por tanto no acabo de ver yo cuál es el título competencial a partir del cual el gobierno pueda intensificar

en el sentido de que aliente al resto de las instituciones a que cada una de ellas active sus mecanismos competenciales

para atender a esta necesidad a la situación de necesidad generada en ondarroa como consecuencia de esta desgracia

eficacia cuando se proyecta sobre recursos propios e instituciones que dependen de uno mismo

se trata de articular actuaciones administrativas dispersas con organizaciones cada una de las cuales tiene sus propios recursos y sus propias competencias

de una potencia y de una capacidad de operatividad relativa claro usted en su interpelación plantea también la posibilidad de atender

de compensar incluso los daños particulares que hayan podido experimentar las viviendas

a ver el mecanismo más común más conocido de compensar económicamente a los ciudadanos y ciudadanas por los daños que hayan experimentado en su

pero opera también exclusivamente cuando los daños son consecuencia directa del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos no es el caso tampoco y desde luego en ningún caso

en fin yo entiendo que usted no criticaba la actuación del gobierno

porque es necesaria inevitablemente la que enmarca la actuación de los poderes públicos en este caso y la que tienen que encauzar inevitablemente

diferentes responsabilidades institucionales de cara a responder al estado de necesidad generado en ondarroa

le tomo la palabra yo le invito a que si usted identifica alguna competencia más del gobierno vasco que pueda activar en esta materia me la recuerde yo la analizaré con mucho gusto pero

kalkulatzen diruak hemendik hara bueltaka gaia konpondu gabe llevamos más de diez años en los que no solo

otra ley de cupo que tendría que haber entrado en vigor en dos mil doce y qué decir

que se modifica para incorporar nuevas figuras tributarias y poquito más diez años en los que el entorno económico y normativo ha variado no solo aquí sino también en el estado y en europa con leyes como la de dependencia que han supuesto modificaciones en la financiación de las comunidades de régimen común

en el cupo o como la ley de estabilidad por ejemplo pero para los gobiernos de madrid como si nada alargando el tema

porque mientras no se soluciona son ellos quienes ganan la verdad es que las discrepancias sobre el cupo

en el que se aprobó la última ley quinquenal en vigor allá por el año dos mil siete son uno de los temas fundamentales en la agenda política de este país discrepancias que ya se han dado en anteriores momentos con anteriores leyes y que desgraciadamente se han venido solventando por las distintas necesidades que han

lamentablemente hemos tenido que ver cómo la liquidación del cupo se ha visto supeditada a la necesidad de aprobación de los presupuestos generales del estado o al apoyo

del partido nacionalista vasco en definitiva hemos visto como algo tan importante para las arcas públicas de nuestras administraciones se ha reducido a un intercambio de cromos entre partidos y esta semana misma ya hemos visto

la misma ecuación cupo presupuestos del estado gobierno del estado partido nacionalista vasco menpekotasuna

sí parece que el cupo ha entrado en juego parece que ha empezado la negociación parece que el baile ha comenzado

el baile lo inicia madrid que es madrid quien tiene la cartilla de bailes y que es madrid quien elige la canción

ha iniciado como la financiación autonómica y ese baile aunque nosotras no lo bailemos puede marcar y puede determinar qué pasa

porque ahí fuera aunque algunos incluso en sus congresos lleven defensas del sistema de concierto económico y convenio navarro sabemos que estos no están bien vistos y que nuestro sistema de concierto se ve como un privilegio a eliminar

ez dela gai txikia la negociación sobre concierto económico y cupo es una de las cuestiones fundamentales que tiene como quehacer este gobierno así lo ha reconocido el propio gobierno y así también lo creemos

porque la autonomía fiscal y financiera es básica para diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades de nuestro país porque son

país por ello queremos saber qué intenciones tiene el gobierno respecto a esta negociación del cupo eskerrik asko eskerrik asko pinedo

urtean hori berretsi zuen por lo tanto señora pinedo es relevante compartir destacar y defender la singularidad de nuestro autogobierno fundamentada

forales el sistema de concierto o convenio vigente ha sido el mejor exponente de la autorresponsabilidad de las instituciones vascas en la gestión económico financiera en el servicio la mejora del bienestar de la ciudadanía

esta ha sido una responsabilidad compartida por todas las instituciones públicas y todos los partidos que hemos formado parte de las mismas aquí presentes tanto en épocas de bonanza

de crisis económica ha sido la filosofía en el ejercicio del sistema del concierto lo que hemos hecho siempre ha sido gastar con arreglo a lo que nos podíamos permitir

y además hemos contribuido puntualmente a los gastos generales del estado a través del cupo esta es la cultura de la gestión responsable de los recursos públicos que se debería impulsar

y para ubicarnos en la realidad actual es preciso recordar que hace poco más de tres años acordamos y llevamos a cabo la modificación del concierto económico en enero del año dos mil catorce se concertaron nuevas figuras tributarias en un total de siete nuevos impuestos

en la concertación no fue posible avanzar en mayor medida quedaron pendientes las discrepancias en materia de cupo que se venían arrastrando desde el año dos mil ocho por cierto es preciso recordar que con motivo de este acuerdo en enero del dos mil catorce

participó también la representación de la diputación foral de gipuzkoa en aquel momento gobernada por bildu subrayo este caso de pragmatismo realismo y atención a la política real

ni tan siquiera ha sido posible el encuentro son conocidas las discrepancias que venimos arrastrando sufriendo diría yo desde dos mil once en materia de liquidaciones de cupo estas discrepancias en la cuantificación del cupo se deben fundamentalmente a la aplicación del índice de actualización del cupo que se refiere el artículo diez de la ley quinquenal

el gobierno español lo ha determinado unilateralmente un nuevo índice de actualización ha aplicado

para el cálculo del cupo desde el ejercicio dos mil once y no se han aplicado las previsiones de la disposición adicional quinta sobre la prevista revisión del cupo del año base

el gobierno español ha asumido al menos la necesidad de sentarse escuchar y hablar sí le puedo asegurar que la actitud del gobierno vasco va a ser positiva

vamos a redoblar los esfuerzos con el fin de resolver las discrepancias existentes en esta materia hemos tenido algún avance

del grupo de trabajo para el análisis y planteamiento de soluciones a las discrepancias

ha sido en el marco de ese foro en el que el gobierno vasco ha tenido la oportunidad de presentar y documentar la cuantificación exacta de la discrepancia

diría que lo es también para todas las instituciones políticas del país y para la sociedad vasca en su conjunto y ante esta nueva situación tenemos una estrategia de negociación

necesario para solucionarlo y reabierta la vía del diálogo bilateral el acuerdo es posible el día quince de septiembre del año

las normas procedimentales el blindaje de las normas no fiscales presenté al presidente del gobierno español una primera propuesta para resolver también las diferencias

ni de negociaciones presupuestarias esta cuestión y la propuesta para la renovación de un nuevo cupo forma parte de la agenda vasca cuentan con el respaldo unánime de esta cámara y la seguiremos planteando al gobierno español todas y cada una de las veces que tengamos ocasión el concierto económico es la piedra angular de nuestro autogobierno afortunadamente el reconocimiento y defensa del concierto económico

concita la unanimidad de toda la representación política e institucional de euskadi y sobre esta base

este es un empeño que mantengo como prioritario al margen de lo que puedan ser empeños de partidos políticos es empeño

ahora bien en cualquier caso le diré que más allá de la falta de acuerdo en relación a la liquidación de cupo mi deseo es que seamos capaces de convertir este debate en una propuesta positiva y constructiva que subraye lo que nos une el compromiso de proteger el autogobierno vasco

la defensa del concierto económico y su explicación no es algo que corresponde única y exclusivamente al gobierno es una responsabilidad de todas y de todos del conjunto de la sociedad vasca

y a la colaboración y a la colaboración también con la sociedad civil

kontzertuaren lagunak gurea kontzertua que se presenta públicamente el próximo día veintiocho de febrero eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

y hasta ahí puedo leer ez dut gehiagorik entzun zer nolako

es cierto y ha hecho finalmente un llamamiento al trabajo conjunto y a la colaboración pero respecto a una fecha concreta

no creo que estaría de más hacer un llamamiento al trabajo conjunto y la colaboración de todos los que estamos aquí y de este parlamento

como tiene que salir yo entiendo su empeño como gobierno que me diga que es un empeño como gobierno pero claro una se siente

no sé nerviosa no nerviosa sino

ayer mismo vemos o hoy mismo hemos leído titulares de prensa

en los que vienen a decir que la ley de cupo pende de la que pase con los presupuestos generales del estado y a mí eso me inquieta me inquieta mucho porque estamos hablando de unos presupuestos generales del estado

influyen en nuestra sociedad y que no influyen para nada bueno para nada bueno y una vez más bueno sí usted me dice los partidos harán lo que tengan que hacer

yo eso en duda como usted ha dicho eusko alkartasuna en su momento estaba y evidentemente colaboró y euskal herria bildu en la última

evidentemente cuando estamos en las instituciones sabemos a lo que estamos y nosotras y nosotros somos responsables de nuestros actos y por eso lo hicimos pero la realidad es que ahora mismo está sobre la mesa esa vinculación entre

presupuestos del estado y una vez más porque esto no es nuevo esto ha pasado infinitas ocasiones lo he dicho en mi primera

y la consejera también que han estado muchos años en madrid eso estaba ahí estaba ahí

con el gobierno de turno partido popular o partido socialista tanto monta monta tanto isabel como fernando me da lo mismo pero es que eso se daba así y claro cuando uno lee el pnv siempre defiende los intereses del bienestar de los vascos y resulta que

año dos mil diez la reforma laboral se aprueba gracias a la abstención del pnv

de las pensiones con el voto a favor del partido socialista socio de gobierno y con la abstención del pnv

cuestiones que nos benefician a todos los vascos y las vascas pues una se inquieta se inquieta porque no lo ve por qué no lo ve porque no son cuestiones

que nos vengan bien a los vascos y vascas que vivimos en este país e insisto tiene que ser una negociación con un punto de vista de país y lo he dicho en mi primera intervención la autonomía fiscal y financiera son básicas

son básicas para que construyamos país para que miremos hacia adelante y pongamos unas bases

sí es cierto que todos aparentemente estamos en defensa del concierto económico algunos como meta y otros

esa es la diferencia que tenemos respecto al concierto económico y para nosotros admito

una meta por lo tanto señor lehendakari cómo va a abordar esta negociación el gobierno

del cupo en este caso el gobierno para que realmente sea una decisión de país una decisión

más le inquieta es la capacidad de negociación que pueda tener el grupo vasco en el congreso y en el senado ante la capacidad de negociación que pudieran tener los representantes de eh bildu también

insisto en lo que le he dicho en mi primera intervención esta es una cuestión de la agenda vasca del gobierno vasco y es una cuestión que entra en lo que es el proceso de negociación del grupo de trabajo ya constituido entre el gobierno vasco y el gobierno español

en cualquier caso sobre la estrategia de negociación déjeme que responda a lo que pueda ser la estrategia de negociación en el propio seno del grupo de trabajo entre el gobierno vasco

afectando a una cuestión como es la que corresponde a la comisión mixta de concierto económico también

con el concierto económico y con la negociación de la liquidación del cupo y una nueva ley quinquenal del cupo es

como gobierno creo en la institución del concierto como instrumento vertebrador de nuestras relaciones económico financieras con el estado y también en sus potencialidades que son las que antes he explicado también que le expuse al presidente del gobierno español en mi reunión del quince de septiembre del año dos mil catorce en sus potencialidades como elemento de convivencia político e institucional

en lo económico reafirmo que el gobierno vasco y las diputaciones forales son las instituciones legitimadas para negociar y acordar con el ejecutivo del estado el contenido evolución y posible actualización del concierto económico que no debemos olvidarlo es una norma estatal que parece también que se olvida frecuentemente que el concierto económico

reafirmo que en tanto constituye uno de los principales activos de nuestro autogobierno debemos esforzarnos en la defensa del concierto y en su actualización

en su primera intervención de la política fiscal para que pueda cumplir su finalidad de garantizar la suficiencia financiera del conjunto de las instituciones vascas el propio acuerdo de gobierno reitera estas ideas

y este acuerdo nos compromete a denunciar y rechazar

una intervención sobre la política financiera y fiscal sin respetarlo y sin acordar en el seno de las comisiones bilaterales

hemos iniciado con el gobierno español un espacio de interlocución constructiva y leal después de mucho tiempo de distanciamiento y desencuentro los equipos de trabajo creados han de trabajar

en un escenario orientado a acercar el acuerdo yo creo en el concierto creo en el pacto creo en el acuerdo bilateral y creo que el acuerdo bilateral es posible

presidente andrea señor lehendakari señores consejeros señor erkoreka

hace unos días se descolgó con unas declaraciones verdaderamente sorprendentes fueron sorprendentes porque fue un argumento

y de hecho esa sorpresa generó titulares de prensa y sorprendentes también porque los datos objetivos no avalan esas manifestaciones viene usted a decir que

de galicia provoca que las obras del tren de alta velocidad en galicia vayan más rápido que en euskadi

si los hechos no lo avalan y este es un argumento nuevo

proyecto de presupuestos una pregunta pertinente podría ser pensar que quizás el subconsciente le ha jugado una mala pasada y que de cara a los próximos presupuestos

además de analizar el contenido objetivo por parte de los grupos de la oposición también tendremos que interpretar si determinadas decisiones son fruto del lugar

si usted cree que esto es uno de los argumentos o una de las medidas que tendremos que tener en cuenta los parlamentarios a la hora de analizar los presupuestos si el lugar donde nacen los consejeros por ejemplo la señora tapia

lamento señor sémper que usted centre la atención en una cuestión muy puntual

por supuesto usted es libre de configurar sus iniciativas como bien desee pero ya veo que no ha escuchado mis palabras

inspirando en fuentes secundarias titulares de prensa y teletipos en cualquier caso me sorprende que le sorprenda a usted

se pueda escuchar una hipótesis sobre lo que está ocurriendo con las inversiones en relación con la alta velocidad en el estado español que se puede calificar de cualquier cosa menos de original rompedora y novedosa porque ha sido repetida en multitud de ocasiones por un sinfín de actores políticos institucionales mediáticos a todo lo largo y ancho de la geografía española

existen estos rumores fíjese un breve repaso por la hemeroteca

europarlamentario catalán denuncia en el parlamento europeo que presupuestos del estado

el ave de galicia recibe más inversión que todo el corredor mediterráneo dos mil doce la inversión del ave a galicia para las obras del resto del fomento del país

en sus propias palabras un ciento treinta y tres por ciento más que en el resto de españa la vanguardia dos mil catorce se ha llegado a escribir negro sobre blanco señor semper seguro que no se le oculta que afirmar

en relación precisamente con este asunto no es una ocurrencia de erkoreka es un clamor como puede usted comprobar en este relato en esta relación que se podría enriquecer

expresando su legítimo orgullo por otra parte de que los nacidos en el país dan prioridad

es un clamor señor semper eskerrik asko

tengo tendencia a fijarme en los detalles señor erkoreka y además le sigo con interés créame con interés y fui a ver la intervención porque digo esto no lo ha podido decir josu erkoreka es un señor serio y responsable

al portal de transparencia del gobierno de españa y en el periodo comprendido entre los años dos mil once y dos mil dieciséis las inversiones en esta materia en euskadi

los dos cómputos claro si el gobierno vasco acudía a los foros donde van los presidentes de comunidades autónomas ustedes tendrían la oportunidad también de escuchar

señor erkoreka y desde el respeto que sabe que le tenemos personal pero bueno esto no es relevante en esta cámara pero también el respeto político que a usted probablemente le guste más el parlamentarismo le guste más el legislativo que el ejecutivo y al final tiene tendencia también a actuar como portavoz de la oposición nosotros le vamos a ayudar queremos ayudarle queremos ayudarle a que vuelva a estar en la oposición

le queremos decir que la información un responsable político

pues a la hora de manifestarse y sobre todo en medios de comunicación de ámbito nacional también en los vascos obviamente pero creemos y usted seguro que comparte conmigo que tiene que manifestarse con cierto rigor que

también tiene que haber rigor pero bueno está sujeta a más veleidades verdad aquí qué nos vamos a decir unos a otros aquí

vamos a centrarnos en la política vasca señor erkoreka déjese de los rumores de lo que dicen otros de lo que

porque anda que los valencianos también se van a poder quejar del tren de alta velocidad verdad no parece que tenga mucho sentido esa queja

presenta unos presupuestos la semana que viene en la que por encima de estos dimes y diretes se abordan importantes infraestructuras como la línea del metro en bilbao como la modernización

racionalización y modernización de la administración pública contará con el partido popular pero trascendamos de los zurrumurrus estos de los rumores de las manifestaciones que hacen unos y otros
y centrémonos en lo objetivo y así seguro que tenemos mucha más capacidad de acuerdo e interlocución señor erkoreka eskerrik asko sémper jauna erkoreka jauna zurea da hitza

no me ha quedado claro señor sémper si usted se presta a arrimar el hombro para aprobar el presupuesto o para echarnos a la oposición que no acabo de ver exactamente cuál es la coherencia entre ambas cosas en cualquier caso yo le puedo aportar también muchos datos objetivos en relación con la discriminación de la que ha sido objeto euskadi y otros territorios en relación con galicia en el capítulo de las inversiones en el tren de alta velocidad pero francamente

yo creo que la ciudadanía más que debatiendo sobre estas pitas menores insisto que está usted haciendo referencia a un

que se le nota no la ha leído la intervención entonces tampoco ha hecho constancia de que yo hice esa referencia porque mi intervención se produjo inmediatamente después

controlada por el pp pues tuvo una entrevista mucho más larga que la mía y expuso con orgullo cuál es el resultado de su gestión

concluidas en galicia y nosotros en euskadi desafortunadamente nadie está en condiciones de afirmar que estén ni en el dos mil diecinueve ni en el dos mil veinte ni dos mil veintiuno ni dos mil veintidós

la ciudadanía nos quiere mejor colaborando por tanto como mañana la consejera estará con el ministro y seguramente usted intentará un momentito para sacarse la foto con él ayúdeles a convencerle

gailegorik unibertsalenak dirudizuela hau da airbag eko gailegoak esanaz lo mismo te digo una cosa que te digo la otra

sustatzen behin eta berriz lo mismo te digo una cosa que te digo la otra hirugarren ildoa

hau bezalako azpiegiturarik no hay una obra más auditada y más fiscalizada que esta

lo fiscaliza el estado español lo fiscaliza el gobierno vasco no hay duda

organizado y además nos apoyamos en nuestras herramientas propias para hacerlo una realidad porque creemos de verdad que el autogobierno y la forma de gestionar desde aquí

lo queremos hacer y utilizamos todos los canales de transparencia que están habilitados para ello pero también la capacidad de gobernar o la necesidad de gobernar es

tomar las decisiones adecuadas este proyecto ha sido debatido de manera democrática por algunos mientras que por otros ha sido desde luego

y el nivel de debate que algunos quisieron imponer en este país pero insisto y usted misma lo ha llevado al lugar que le corresponde este debate está superado

es la preocupación de todos y todas es en qué momento y cómo va a llegar a nuestras capitales nos va a conectar con iparralde con francia porque vamos a llegar hasta irún cuándo nos va a conectar con navarra en qué condiciones con nafarroa con iruña

de verdad cuándo vamos a tener unos servicios

ese es el debate y esa es la preocupación de la sociedad

y dejarnos desde luego de escenarios pasados que ustedes quieren volver a recuperar cuando desde luego lo pusieron en marcha de una forma no excesivamente democrática

aquí y la sociedad lo que nos pide es cómo cuándo en qué condiciones y que seamos realmente hábiles y que demos respuesta a las necesidades porque es cierto que las infraestructuras que tenemos las tenemos que mejorar pero esta es complementaria y responde a unas necesidades

el debate sobre nuevas infraestructuras o grandes infraestructuras me perdonan pero nunca estará superado creo que

en los últimos veinticinco además años así lo atestiguan a título de ejemplo le voy a comentar unas cuantas cosas aspectos que se han trabajado reestructuración sectorial

la mejora genética en nuestras reses para que sean más productivas y para que realmente

además hemos dado asesoramiento específico a esas explotaciones con centros de gestión específicos de forma continua y además de centros de formación y de gestión toda esa investigación tecnológica que se realiza en los centros específicos se transfiere a esos lugares la política

en cuanto a gestión medioambiental por tanto esa es la forma de trabajar y vamos a seguir trabajando con agraria no lo vamos a hacer obviando la profesionalización del sector necesaria y su competitividad pero sí apoyando sobre todo a esas

me gusta oír un no rotundo la verdad es que es difícil que este gobierno se pronuncie en varios temas y en muchos temas pero hoy he oído un no rotundo así que yo confío en ello en este caso la verdad es que

porque hay que liderar una oposición clara hay que liderarla lideran tantas cosas bueno pues en este caso una oposición clara

aquí menos mal a los montes parece que he oído no también hay modelo industrial aquí

animales donde los trabajadores donde las trabajadoras no son ganaderas y pasan a ser únicamente números de hecho ni siquiera esta macrogranja es bueno de hecho esto ni siquiera es una macrogranja ni una granja incluso

ambiental brutal no solamente hacia al medioambiente también hacia las personas y hacia el mercado que no se nos olvide que esto va a bajar va a tirar los precios no este tipo de explotaciones intensivas como decía con menos animales también son intensivas no hace falta poner un número de veinte mil muchas menos aquí también las tenemos muy cerca

necesitan por decir un dato seis millónes de litros de agua al día no quiero pensar

ni cómo lo van a hacer con el purín medioambientalmente desde luego es una catástrofe

ni de unos modelos intensivos que también los tenemos ya y los tenemos aquí mismo además pedir responsabilidad y pronunciamientos claros que la verdad no es nada original pero a mí hoy no me toca ser original me toca simplemente

decía que se ha hecho una apuesta en los últimos veinticinco años cierto últimos veinticinco años en la que

ha sido brutal y que por decir un dato así en el último año y medio en el estado español han caído dos mil explotaciones no sé si eso es un apoyo al sector

en su mano está consumir con sentido común en la mano de todos y todas está saber qué estamos comiendo

yo lo llamaría trazabilidad social qué estamos comiendo de dónde viene y quién los produce no en ese caso también yo creo que la sociedad tiene mucho que decir y de dónde va a comprar la leche que sale

voy acabando esta granja desde luego no es la leche una campaña que sacan los sindicatos y desde luego la vamos a apoyar

el mercado actual y que va a crear unas condiciones más que indignas no solamente para las personas que trabajan en las exportaciones sino para los animales

que cuidan que mantienen no solamente la tierra los pueblos y la cultura así que solo le pediría ya en los últimos segundos señora tapia
vamos a declarar nuestro territorio libre de modelos industriales en los que también cabe granjas más pequeñas gracias eskerrik

señora lópez de arroyabe lo de libre de modelo industriales me lo va a tener que explicar un poquito mejor porque si décimos que de verdad es un sector económico y un sector que tiene que ser rentable

de forma de trabajo y de profesionalización no estoy hablando de dimensión

mediana y terrible a veces gure ustiategiak orokorrean esne behietakoak

ahora hace mucho tiempo a través de cooperativas de asociaciones de ganaderos como usted bien sabe y gracias a eso el sector lácteo que se ha visto en muchísimos problemas a lo largo del último año y me decía usted

han desaparecido en el estado español me decía creo que responsabilidad en el estado español todavía no me han dado pero bueno nosotros procuraremos trabajar con las nuestras que también han tenido dificultades y problemas pero desde luego a través de todas esas actuaciones en supresión de cuotas lácteas que se ha producido en europa nuestro sector también se ha visto sin embargo gracias a ese trabajo en cooperativas y en asociaciones todavía nuestro sistema está funcionando un poquito mejor y

es mucho más elevado que en otros lugares y gracias por el

a que nuestras familias nuestras cadenas distribuidoras compren producto local y sigan haciendo promoción del mismo eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

bat direla formulamos desde el grupo popular esta interpelación el primer cara a cara señora consejera que tengo con usted en relación a un tema absolutamente prioritario y que consideramos que tenía que ser absolutamente prioritario en la acción a desarrollar

gobierno no solo a lo largo de estos cuatros en la esta legislatura que hemos comenzado sino que tenía que haber sido

años pasados pero tenemos muchas dudas al respecto por los hechos que se han sucedido a lo largo de los últimos cuatro años en relación a las políticas de familia y las medidas

no ha impulsado el informe del ararteko de las políticas de apoyo a las familias en euskadi del año dos mil catorce constituye desde luego una radiografía muy gráfica de la situación de las políticas de familia

hay datos sin duda que para nada llaman al optimismo

se nos dice en este informe cosas que ya sabemos pero que quedan reflejadas con datos

del resto de europa y que esta cuestión está directamente relacionada con las dificultades que tienen las familias para la conciliación se habla de la edad de emancipación

no han podido comenzar un proyecto vital propio se hace referencia también a otro dato muy llamativo cómo el diecisiete por ciento de las familias con un cabeza menor de treinta y cinco años no tienen los hijos que les gustaría por motivos económicos o por no poder cuidar a sus hijos

por recordar también la carta social europea en el artículo dieciséis reconoce en el ámbito del derecho

la relevancia de la protección social jurídica y económica en relación al marco jurídico en euskadi

que sin duda establece un marco y las bases para el diseño de esa política integral orientada

y la vida en definitiva de las familias y sus miembros por lo tanto los poderes públicos tienen un mandato expreso de establecer ese marco adecuado

entre las que sin duda destacan las medidas de apoyo económico para que las familias puedan atender todas las necesidades que tengan que ver con el cuidado de los hijos

consejera sabe hay un título específico a las medidas de protección atención y apoyo a las familias un capítulo

destinado a las ayudas a la conciliación posteriormente esta ley del dos mil ocho se ha ido desarrollando en numerosos decretos pero nosotros tenemos que decir y al comienzo de esta legislatura y por eso nos ha aparecido oportuno traer un debate que preocupa a los ciudadanos vascos

teniendo en cuenta los problemas estructurales que tenemos con el nacimiento en euskadi los índices de natalidad el envejecimiento de la población

que en vez de ir hacia delante en la línea de los establecido

dos mil catorce y ustedes han tenido un tiempo para hacer esa reflexión y para poner medidas en la línea de las conclusiones y las recomendaciones manifestadas en dicho informe

en vez de ir hacia adelante hacer esa reflexión un diagnóstico

concretas han ido en sentido contrario esto ha sido muy llamativo cuando

pasada legislatura y al principio de la legislatura señalaba que el gobierno su gobierno el gobierno que él presidía era el gobierno de las

era el gobierno de las personas y que tenía como eje primordial de la actuación

del gobierno y de su acción política a las personas hay que decir claramente que en política de familia a lo largo de los últimos cuatro años señora artolazabal hemos retrocedido

no ha habido avances en la línea de las recomendaciones del informe del ararteko y eso que este informe es del año dos mil catorce ha habido recortes en las ayudas concretas dirigidas a las familias vascas las ayudas a la conciliación en el presupuesto del dos mil catorce

presupuestada destinada a las ayudas a conciliación eran diecisiete coma tres millónes de euros es decir la mitad de la cantidad presupuestada en los presupuestos anteriores

en relación a las políticas de conciliación en la partida concreta en relación a los presupuestos anteriores

obviamente al reducirse la mitad el presupuesto no pudieron atender a todas las solicitudes y ustedes tuvieron que dictar una resolución específica

del crédito pero es que además con esa cantidad que ustedes habían previsto de diecisiete coma tres millónes de euros solo les llegó para satisfacer las

el mes de enero y febrero aunque posteriormente intentaron enmendar

situación que ustedes arrastraron porque desde luego tuvieron que pagar todas aquellas solicitudes que se quedaron sin atender ya desde el año dos mil catorce el primer año del gobierno del señor urkullu pero más es que en los cuatro

del gobierno vasco se ha reducido la cuantía de las ayudas subvenciones y prestaciones económicas ello se ha reflejado a través de una disposición adicional que iba acompañada a todos los presupuestos que hemos aprobado que ha aprobado esta cámara

la pasada legislatura es decir se recortaban específicamente a través de una disposición adicional las ayudas a las familias y las ayudas a la conciliación

o muy pocos de los objetivos fijados en relación a las ambiciones

pero es que le voy a decir más la pasada legislatura en marzo este grupo y esta parlamentaria formulamos al consejero entonces toña una interpelación en relación a qué iba a pasar una vez acabada la vigencia del tercero plan de apoyo institucional a las familias

y nos decía el señor consejero que ustedes estaban trabajando en un ambicioso plan de familia en una nueva estrategia en un plan

interdepartamental interinstitucional cuyo borrador estaba ya en posesión del gobierno vasco

consejera en el traspaso de poderes el señor toña le ha pasado ese borrador de ese plan estratégico me imagino que sería el mismo plan estratégico

bombo y platillo también en marzo a propósito de unas jornadas de paternidad compartida en vitoria en las que también iba acompañado del señor toña

no sé si se refería al mismo plan o ese anuncio

propaganda electoralista teniendo en cuenta que teníamos las elecciones a la vuelta de la esquina por eso señora consejera tenemos muchas dudas

necesarias en euskadi los próximos cuatro años usted mismo recientemente en la comparecencia a propósito de la explicación de las líneas maestras de su departamento señaló que iba a aumentar hasta un cincuenta por ciento el dinero para garantizar los recursos mínimos a las familias desde luego vamos a estar muy atentos

en los presupuestos porque no ofreció mayores concreciones visto todo esto

y por eso desde el grupo popular le formulamos la siguiente interpelación si es propósito del gobierno seguir con los recortes que han sufrido las familias vascas a lo largo de los últimos cuatro años de legislatura del gobierno de urkullu

legebiltzarkideok egun on guztioi comparto con usted señora garrido la importancia que tiene la familia

y con el tiempo va adecuándose a los cambios y avances que vivimos le recuerdo señora garrido que las ayudas por nacimiento son consideradas derecho subjetivo por lo que su afirmación

no es cierta ni se puede dar estas ayudas se conceden a todas aquellas familias que tienen derecho a las mismas en concreto el número de ayudas para la conciliación se ha incrementado este último año dos mil dieciséis situándonos en niveles similares a los del año dos mil trece se han

en cuanto a los expedientes referidos a las ayudas por hijos e hijas estos se mantienen similares a los realizados en los últimos ejercicios

tenga en cuenta que los decretos que regulan las ayudas a las familias han incorporado la perspectiva de la renta

se crea un parámetro común y ponderado para el cómputo de las rentas familiares y así se asigna un trato más equitativo a los distintos tipos y situaciones familiares en aquellas ayudas familiares o servicios de apoyo a las familias en los que el nivel económico de renta de la unidad familiar

o como criterio para la determinación de la cuantía ello de acuerdo con la idea de que un mismo nivel de ingresos no ofrece similar capacidad económica

los beneficios que aporta la aplicación de este nuevo modelo y que a su juicio podría ser adoptado por otros sistemas esta mejora de los decretos supuso un cambio en el procedimiento y gracias al esfuerzo del departamento a día de hoy se han superado los retrasos

creo que está claro que cuando hablamos de apoyo a las familias no debemos limitarnos a las ayudas económicas es necesaria una visión amplia que dé respuesta a las necesidades de todas las familias

en las estructuras familiares se ha producido una revolución silenciosa protagonizada por las mujeres y su acceso a la participación social plena lo que ha generado

en la edad de emparejamiento y en la fecundidad a esto hay que añadir un importante hándicap

se implican en la participación del trabajo doméstico o en el cuidado de personas dependientes dentro de las parejas la responsabilidad sigue cayendo en las mujeres

de un contrato a tiempo parcial el resultado es que las mujeres que buscan estrategias de conciliación de la vida familiar y laboral se ven obligadas a abandonar el trabajo remunerado o a ajustarlo a reducir el número de hijos o a no tenerlos buscar un servicio de apoyo tanto doméstico para las tareas del hogar o de cuidados a los familiares dependientes al igual que sucede en los países de la europa más avanzada este es el escenario demográfico

agravado por la crisis económica que hemos padecido en euskadi la tasa de natalidad ha vuelto a reducirse llegando a los niveles de dos mil dos

respectivamente y es la evidencia de que la caída de las tasas de natalidad está estrechamente ligada al ciclo económico la causa fundamental

está relacionada con las condiciones que favorecen u obstaculizan el nacimiento del segundo hijo o hija y de los siguientes porque los problemas de conciliación relativamente limitados a un único hijo aumentan de forma decisiva con dos y más las preferencias colectivas se articulan por tener dos hijos lo que requeriría servicios de guardería como medio esencial para reducir los costes de oportunidad de la maternidad

con bajas de maternidad que por ser breves o largas no inhiban la vuelta al trabajo y con ayudas a los ingresos a través de subsidios familiares se supone que cada nueva hija o hijo comporta un aumento del veinte por ciento del consumo de la familia todo lo que afecta a la vida de las personas y a las familias

tiene incidencia en la decisión de las parejas y de las mujeres sobre el momento de afrontar la paternidad y la maternidad sobre el número de hijos e hijas que se deseen tener llegados a este punto entendemos que las políticas destinadas al apoyo a la natalidad

y que los ámbitos de actuación abarcan toda la acción de gobierno

como son la promoción del empleo de calidad igualdad de acceso de mujeres a todos los ámbitos de actividad educación sanidad guarderías horarios laborales que faciliten la conciliación

es por ello que consideramos que el debate de las medidas de apoyo a las familias ha de ir más allá de las ayudas económicas cierto es que el grueso del presupuesto del área de familia va destinados a estas ayudas veintisiete coma cinco millónes

pero quisiera también poner en valor los programas de parentalidad y conciliación corresponsable que se desarrollan desde el departamento hemos iniciado un proceso de reflexión sobre esta cuestión que entendemos ha de ir más allá de la mera previsión presupuestaria de una determinada ayuda económica

siempre son bienvenidas pero hay que evaluar su efecto si es socialmente más conveniente invertir en todas las familias por igual o sobre las que tienen dificultades económicas o si es más efectivo facilitar ayudas a la conciliación que las ayudas por hijos e hijas el modelo de gasto de prestaciones económicas de apoyo a las familias de rentas bajas vigente en euskadi

al de los países de la unión europea de nuestro entorno nuestro reto consiste también en articular medidas que apoyen a las rentas medias pero el problema se sitúa

antes el debate consistía cómo asegurarse de que las mujeres que trabajan tendrán hijos el debate es menos natalista y la formulación del problema sería cómo asegurarse que las mujeres que quieren tener hijos no tengan que sacrificar su carrera profesional para tenerlos

facilitando la generación de un ambiente familiar positivo la literatura científica disponible apunta a que la mejora de las capacidades parentales se relaciona

tenemos el convencimiento de que representa una inversión crucial para el futuro de europa y de euskadi y así como una contribución directa a la estrategia europa dos mil veinte para que sea un crecimiento inteligente sostenible e integrador ello presenta beneficios a largo plazo para la infancia la economía

es justo rentable y beneficia a todos ya que promueve el desarrollo económico y social al aumentar la productividad y garantizar un crecimiento sostenible

hasta un cincuenta por ciento de las ayudas destinadas a las familias con hijos e hijas

yo creo que la afirmación que usted realiza no es cierta no se ha producido recortes

una disminución de las aportaciones en la partida de conciliación

hizo un esfuerzo que se materializó en los siguientes presupuestos aumentando la cuantía en el presupuesto de dos mil quince hasta treinta y uno millónes trescientos setenta y siete mil euros y en el presupuesto del dos mil dieciséis

es decir pasamos de diecisiete millónes a treinta y dos coma cinco millónes dígalo todo señora garrido además

en el ámbito de las ayudas a las familias como usted bien sabe es un derecho subjetivo en el que

solicitudes que las familias hayan realizado por el nacimiento de sus hijos

para desde el departamento actualizar las demandas que se habían quedado retrasadas y en este momento le puedo asegurar que estamos en los niveles similares a las que se estaban realizando en los años anteriores siendo en el año dos mil dieciséis los expedientes abonados

realizaron en el dos mil quince por tanto señora garrido el esfuerzo de este gobierno y del lehendakari a la cabeza es apostar por las familias nosotros

realizaremos esa estrategia que anuncie en la comparecencia que nos determinará y nos diseñará cuáles son las líneas estratégicas y las aportaciones económicas

gracias señora presidenta bueno señora artolazabal lamento que no siga estando el lehendakari

interesante sobre todo para un gobierno cuya prioridad son las personas pero

credibilidad ninguna no puede tener y este grupo no puede tener credibilidad

en un gobierno usted aquí nos está hablando que va a incrementar las ayudas en un cincuenta por ciento

que se marcan en los propios presupuestos y luego tienen que venir los recortes y las inejecuciones presupuestarias como llegaron en el dos mil catorce cuando se recortó a la mitad la partida de las ayudas a la conciliación efectivamente las ayudas por nacimiento es un derecho subjetivo

no quiere decir que no estén sujetas al recorte del siete por ciento como también lo están las ayudas de la renta de garantía de ingresos que están sujetas al recorte del siete por ciento y sino

de todos los presupuestos en los que se habla de recortes en las ayudas subvenciones y prestaciones económicas y se hace una referencia también expresa a las ayudas a la conciliación

no ha garantizado que este gobierno no haya hecho recortes en las ayudas

no podemos tener confianza en un gobierno que en el primer presupuesto diciendo que era el gobierno de las personas recorta las ayudas a la conciliación a la mitad

que se quedaron sin atender porque ustedes bajaron la persiana y fue en agosto

y se dejaron de atender las solicitudes desde febrero

las de ese año la de los dos primeros meses por otra parte el recorte

y también en la rgi que es derecho subjetivo y también en las ayudas por nacimiento que es derecho subjetivo y en las ayudas por la conciliación de forma expresa claro usted no pretenderá que creamos en las intenciones de este ejecutivo

en el ámbito social y usted nos está anunciando hoy aquí que vamos a aumentar las ayudas en un cincuenta por ciento

ya pronto a la cámara por lo tanto me imagino que tendrá en su cabeza las cifras

en las partidas concretas previstas que tienen que ver con las políticas

y también y si van en esas partidas que se incrementan ese cincuenta por ciento si usted hoy aquí adquiere el compromiso

a la conciliación de no recortar esas ayudas y no

y su ejecutivo en el que usted ahora es la consejera de asuntos sociales y empleo

reducida a la mitad por lo tanto vemos otra vez demasiada autocomplacencia porque ustedes

que se erige el gobierno de las personas no puede llegar a la primera de cambio

esos ajustes presupuestarios por inejecuciones presupuestarias es en las políticas sociales y en las políticas

poca credibilidad cuando un gobierno incumple sus propias promesas

hace anuncios absolutamente electoralistas

que se los lleva el viento porque el señor lehendakari nos habló de una estrategia

de inversión de apoyo a las familias por un importe de doscientos millónes de euros que no sabemos dónde está y eso que el señor toña su predecesor le dijo que tenía dijo en esta cámara que tenía

que sepamos claramente las intenciones de este gobierno pero no solo lo que va a ir en los presupuestos

que va a diseñar este gobierno para los últimos cuatro años cuáles son sus intenciones

también de cumplir las cantidades correspondientes presupuestarias qué modelo van a seguir yo creo que nuestro presidente se lo ha dicho en la primera pregunta

ustedes tienen que tener claramente las prioridades y las prioridades para el partido popular están muy claras hoy le hemos dejado aquí encima de la mesa una las políticas de familias que no sigan ustedes con los recortes si van por esa línea

gracias señora presidenta señora garrido

cuando usted dice el siete por ciento de recorte le quiero recordar que ese recorte se produjo

pero con el apoyo del partido popular sí yo se lo quiero recordar que ese gobierno fue apoyado

se pudo llevar a cabo porque el partido popular apoyó ese recorte le recuerdo señora garrido que las ayudas por nacimiento son un derecho subjetivo

cuando usted habla debería tener rigor a la hora de utilizar los datos económicos que aparecen en los presupuestos porque son importantes en el dos mil trece

importes abonados por valor de veinte millónes de euros en el dos mil catorce fueron veintinueve millónes de euros nueve millónes seiscientos mil más en el dos mil quince se produjo

pero porque está ocasionado por la baja natalidad porque no existen suficientes demandas porque las demandas son atendidas y en el dos mil dieciséis esas necesidades van a ser atendidas en más de treinta y dos mil expedientes que son las que hemos recibido todas las que hemos recibido ha habido un esfuerzo por parte del departamento a la hora de actualizar todas aquellas iniciativas y todas aquellas solicitudes que habían hecho las familias

los pasos iniciales en la implementación también se produjo una situación que tenemos que tener en cuenta que fue el uso de la renta estandarizada para poder llevar a cabo la adjudicación

pondera la renta familiar según el número de miembros y su composición para aquellas ayudas o servicios de apoyo a las familias donde su acceso y criterios de cuantía de la prestación estén condicionados por la unidad de la renta familiar tal y como se lo he comentado anteriormente y además esta es una demanda

de familias de familias que trabajan en el ámbito de las familias numerosas en concreto nos han solicitado nos han dado la enhorabuena y nos han pedido que se extiendan

prestaciones que se pueden dar por parte de departamentos e instituciones le insisto y le recuerdo señora garrido que uno de los objetivos principales de este gobierno son las familias que el lehendakari así lo ha manifestado que además los hechos demuestran que es así que en la parte de conciliación

que se produjo ese recorte o ese ajuste en el presupuesto

se han actualizado a las cifras que venían ya de los años anteriores y que el presupuesto en el año dos mil dieciséis

y que los expedientes analizados y tramitados

igual o superior a los que se habían tramitado en los años anteriores

de las prestaciones económicas a las familias e hijos y el incremento de la natalidad yo se lo dije en la comisión cuando comparecí

el programa de gobierno y le anuncié que únicamente mediante ayudas económicas puntuales las familias vascas no iban a incrementar la natalidad que teníamos que realizar un cambio cultural en el que todos los agentes económicos los agentes sociales y las instituciones nos implicásemos para llevar a cabo dicho cambio y ese cambio de cultura y hábitos por parte de todos requiere un esfuerzo y tiempo

en el ámbito de la conciliación para que sea corresponsable y que sea un reparto equitativo no le voy a repetir señora garrido ya lo que le expuse en la comparecencia

e invertir en infancia supone atenuar la desigualdad social vinculada a la estructura el apoyo de las familias es fundamental para este gobierno y este gobierno y el anterior ha doblado y consolidado los niveles de inversión en las familias

a treinta y dos millónes en ayudas a la conciliación para nosotros para este gobierno la familia va a ser

prioridades durante el año dos mil diecisiete llevaremos a cabo una estrategia vasca nos determinará cuáles son las líneas de actuación
y a lo largo de la legislatura aumentaremos el eskerrik asko artolazabal anderea

tejeria anderea como sabe usted señora san josé el

mi pregunta es si usted considera que el establecimiento de servicios mínimos del cien por ciento en aquel caso por parte del señor consejero señor toña respetan el derecho de huelga de estas trabajadoras muchas gracias

señor hernández en la pregunta que formula parece que está pretendiendo establecer una contradicción entre el derecho a la huelga y los servicios mínimos establecidos para la convocatoria

vaya por delante que esta consejera cree firmemente en el derecho a la huelga y no dictará nunca una orden que vulnere ese derecho

la orden que regula los servicios mínimos no ha sido recurrida y no lo ha sido porque

el tribunal constitucional intentó una definición de los servicios esenciales

para que el servicio sea esencial deben ser esenciales los bienes intereses satisfechos

hay que considerar los derechos fundamentales las libertades públicas y los bienes constitucionales protegidos

que una de las dificultades del sistema español y la jurisprudencia constitucional sobre este asunto que es la huelga es precisamente la delimitación de esos servicios esenciales pero creo que

resulta imprescindible para responder a necesidades vitales y es por ello que la atención de las urgencias de orden público

salvamento marítimo urgencias de servicios sanitarios y otros análogos constituyen servicios esenciales para la comunidad

dicho de otra forma o se atiende o no se atiende el teléfono en situación de emergencia veinticuatro horas al día y los siete días de la semana no hay otra forma

eskerrik asko por su respuesta yo no voy a discutir de

usted sabe más que yo y seguramente también por eso conoce que en el año dos mil dieciséis ha habido varias sentencias

que en casos absolutamente similares han dicho que había

nosotros no cuestionamos que haya que establecer servicios mínimos nosotros lo que sí cuestionamos

del gobierno de que no se pudieran respetar esos otros derechos que

tienen que garantizar los servicios de emergencia que no se pudieran garantizar con unos servicios

al cien por ciento a nosotros de esta cuestión nos preocupan dos cosas en primer lugar que consideramos porque nosotros pensamos que si usted sale a la calle y le pregunta cualquier persona con un mínimo de sentido común y le dice que trabajadoras han convocado una huelga para reivindicar sus condiciones laborales y que las jornadas de huelga no pueden faltar ni un minuto a la

la mayoría de la gente entenderá que no se les está permitiendo ejercer el derecho de huelga

que nos parece lógica y por lo tanto nos preocupa en primer lugar que creemos que se está violando

de las trabajadoras y trabajadores creemos que no se ha tenido en cuenta a la hora de argumentar que contravenían diferentes derechos no se ha tenido en cuenta un principio de equilibrio

es el derecho de huelga que es un derecho fundamental y en segundo lugar nos preocupa

de trabajo de estas trabajadoras que son las que en última instancia las han llevado a la huelga porque a mí la verdad es que desde bastante pequeño

era digamos la última herramienta a la que recurríamos cuando no se nos había escuchado en ningún ámbito y ninguna de las cosas que anteriormente habíamos hecho

laborales son muy precarias y aquí está la contradicción del gobierno que yo sé que usted no tiene responsabilidad aún en esto pero la contradicción de un gobierno que considera que los servicios que dan estas empleadas son unos servicios esenciales

nada de huelga y a la vez permite que estén en unas condiciones de trabajo precarias un gobierno que por lo tanto entiende que unos servicios esenciales

en condiciones precarias yo la verdad es que seguramente por mi naturaleza ingenua venía aquí con la esperanza de que usted no compartiese la opinión del anterior gobierno

próximas convocatorias similares el derecho de huelga de los trabajadores no sea cercenado con esos argumentos ni con ningún otro porque creo que no se puede defender

mire señor hernández desde dos mil diez se han emitido aparte de la que he mencionado de quince de noviembre

en todas ellas los servicios mínimos son del cien por ciento en alguna se establece que el personal es el equivalente a un día festivo en el caso que nos ocupa el número de personas trabajando es el mismo

en la orden de quince de noviembre se decía como en alguna otra anterior que el servicio de los días

por el personal habitual de cada turno insisto señoría la razón para dictar estos servicios mínimos

y no en un posicionamiento sobre la huelga tengo la seguridad de que las razones para su convocatoria no se han valorado ni a la hora de elaborar la orden de servicios mínimos y que las reivindicaciones que se han hecho tampoco voy a valorar yo ahora el gobierno es garante de los derechos de los trabajadores

que corresponde a la patronal y a los representantes sindicales y ahora además como creo que ya les quedó claro hace unos días a través de los grupos que apoyan al gobierno lo seremos doblemente porque la ley de cláusulas sociales nos permitirá velar

y hoy pretendemos seguir con el mismo sosiego en la pregunta

porque usted nos decía que necesitaba más dinero que había que subir la presión fiscal y básicamente yo por lo que he leído en la prensa hablaba usted del impuesto

de ingresos y de recaudación para el dos mil diecisiete que acordaron en octubre de dos mil dieciséis le he oído al lehendakari esta mañana y nos va a traer unos presupuestos en el que se va a incrementar la sanidad la educación las inversiones el fomento del empleo es decir de todo le acabo de oír a la consejera de empleo

y ayudas sociales y nos ha dicho que va a incrementar en un cincuenta por ciento el gasto y por lo tanto

me sorprende que usted necesite más dinero con las previsiones que el lehendakari y

que nos van a traer ustedes yo le diré que en fin que nosotros coincidimos con esa apreciación que hacía usted de bajar el tipo del impuesto

y por lo tanto nosotros hay sí usted está dispuesto a plantearlo le apoyaremos al hacerlo pero por eso yo le pregunto cómo espera recaudar más hombre y también la novedad es y por qué

también con todo el sosiego vamos a hacer los presupuestos que van a crecer muy poco y le va a sorprender a usted cómo vamos a cumplir con los compromisos que tienen el gobierno pero es un hecho objetivo en todo caso que la presión fiscal ha bajado desde el año dos mil siete en dos coma dos puntos hasta hoy

el gobierno ha tenido que sostener y financiar un gasto creciente

la protección social y a la par ha tenido que reducir el déficit público

en el tres coma nueve por ciento debido al desplome de la presión fiscal en cuatro puntos el gobierno no puede ni debe reducir los servicios públicos en situación de crisis porque lo que le toca

y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a seguir haciendo

para contar con los recursos suficientes para llevar a cabo las políticas públicas que el gobierno considera prioritarias

así como la mejora de las políticas sociales esta es nuestra responsabilidad esta es la responsabilidad del gobierno

no hay que limitar el discurso al impuesto de sociedades aunque tampoco se puede negar que este ha descendido en el año dos mil dieciséis en un tres coma cinco por ciento con posibilidad la aprobación de las normas forales del dos mil trece

empresarial me refiero por ejemplo al proyecto de la ocde sobre erosión de bases imponibles y traslado de beneficios

del consejo de la unión europea creo que por ese camino se podría avanzar con el fin de conseguir

a la de los países de nuestro entorno siempre desde el consenso interinstitucional esto nada tiene que ver con las pymes y con la economía real que tienen y tendrán todo

si alguien pretende subir la presión fiscal no parece que el impuesto de sociedades que apenas alcanza el cinco por ciento de la recaudación

que vaya a subir de forma significativa esa presión fiscal verdad por lo menos con los datos que desde el propio consejo vasco de finanzas se nos dan

tiene que dotar de recursos suficientes a las administraciones públicas para prestar los servicios públicos que están obligados y que se merecen los ciudadanos y a lo que tienen derecho ahora bien también se puede gastar menos

lo que está haciendo desde que ha llegado es incrementar los altos cargos del gobierno

que no sé por qué eso hay que financiarlo con nuevos impuestos

y se pueden tener más ingresos fomentando la inversión y ampliando la base de cotizantes por qué cuando el señor consejero se plantea que necesita más recursos no se plantea fomentar que haya más empresas fomentar la riqueza fomentar la creación de empleo fomentar que haya más cotizantes en todos los impuestos en el irpf en el iva que haya más gente cotizando de las que estamos ahora porque eso es lo que nosotros entendemos que tendría que hacer el gobierno

qué impuestos subo más y desde luego claridad efectivamente para las pequeñas empresas y la economía real y las empresas medianas

si usted mismo planteó que había que bajar del veintiocho al veinticinco nosotros lo planteamos eso hace cuatro años pero no nos hicieron ustedes caso

claridad esa medida por ejemplo fomentaría y podría atraer inversiones por qué va a invertir aquí alguien para pagar el veintiocho cuando en otros sitios paga el veinte

claridad sí señor damborenea el tipo efectivo como sabe usted el tipo efectivo no es superior en euskadi

estoy encantado de apuntar las que usted me diga incluso tratar de llevarlas adelante

y aun unas mucho más drásticas la autentica bandera de su reforma fiscal y tampoco entiendo

extractivo pues señor alonso teniendo en cuenta que la presión fiscal

yo no sé cómo califica usted al sistema fiscal español

espero que ustedes no piensen que la gestión institucional es una improvisación institucional si algo tiene de bueno la economía es que los números cantan

no es una isla en una economía global pero para concluir y para

la regulación de los tributos concertados todos somos conscientes de que les corresponde a las juntas generales de los territorios históricos pero el gobierno sí tiene capacidad de plantear iniciativas tributarias en el órgano de coordinación tributaria y así lo vamos a hacer en coordinación con las diputaciones forales

de la reforma de dos mil catorce y como dice no se trataría de suprimir deducciones sino de proteger bases imponibles de la erosión y de la planificación fiscal agresiva

una actividad consolidada una actualización de este tipo debería hacer en nuestra opinión y

un impuesto más moderno más justo y más equitativo como lo tienen muchos países europeos

como lo hemos hecho siempre no le quepa ninguna duda

eskerrik asko de bengoechea andrea

a los sectores y familias profesionales que más necesitan trabajar con él para ello reforzamos el trabajo de los tutores y tutoras de dicha formación para que en el inicio

la financiación del departamento va dirigida a reforzar el trabajo de dichos tutores y tutoras en la fp púbica se establece dicho apoyo a los centros que trabajan proyectos de fp dual

que se asigna a los mismos en el caso de los centros concertados se publica anualmente una orden por la que se convocan subvenciones para desarrollar programas de formación profesional en régimen de alternancia en centros privados concertados de la comunidad autónoma del país vasco

se trabajó con las asociaciones de centros de fp privados que participan en el consejo vasco de formación profesional dicha subvención es el resultado de distribuir la dotación presupuestaria prevista

siempre y cuando no superen los novecientos cuarenta y uno euros de cada alumno y alumna eskerrik asko uriarte

mire le hemos hoy mismo oído al lehendakari decir aquí

y también del gobierno vasco es un más y mejor empleo son palabras textuales porque las he apuntado vamos a ver y resulta que pocos instrumentos más útiles hay para esto que la formación profesional dual voy a dar datos que seguramente usted conoce pero que quizá miembros de la cámara

vamos a ver tengamos en cuenta que la formación dual

en el año dos mil doce dos mil trece cada año prácticamente se han doblado los alumnos que están atendiendo a esta modalidad

vamos a ver los alumnos que tenemos en estos momentos tenemos si no me equivoco

mil doscientos ochenta y tres alumnos estos datos los hemos tenido que sacar nosotros porque están actualizados a dos mil dieciséis dos mil diecisiete y los únicos que hemos encontrado de la consejería

alumnos y las empresas que están involucradas son setecientos noventa pero lo más importante

la evolución en centros públicos

con sesenta y siete empresas involucradas al año siguiente noventa y uno al año siguiente ciento sesenta y siete es decir

las empresas están recibiendo muy muy bien este tipo de formación y los alumnos

antes le he dado de los centros públicos de los centros concertados las empresas pasan de cuarenta a berrogeita bi a ehun eta berrogeita lau

hasta dos mil quince qué quiere decir esto que pocas cosas podemos hacer en euskadi

directamente efectivas tanto en la educación como en lo que se refiere al empleo y la economía porque déjeme darle otros datos que para nosotros han sido importantísimos en dos mil doce consiguieron empleo después de terminar la formación profesional el cincuenta y cinco por ciento de los alumnados tuvieron contratos al año siguiente el sesenta y cuatro

el setenta por ciento y en el último año el setenta y siete coma dos por ciento

la financiación ha bajado terriblemente por alumno desde cinco mil setecientos euros con los dos mil de lanbide en el dos mil trece a los dos mil setecientos en el dos mil diecisiete desde cinco mil setecientos a bi mila zazpiehun por qué porque la cantidad es la misma

en el número de alumnos que se apuntan estamos viendo que la financiación por alumno cada vez es más baja nosotros le pedimos por favor que haga un esfuerzo en este campo por una razón muy sencilla creo que he dado los datos setenta y siete por ciento de alumnos contratados

interesadas y un tema en el que estamos incidiendo en educación en empleo y en economía muchas gracias eskerrik asko

interés y preocupación y apuesta por la formación profesional que usted ha manifestado realmente

somos referentes realmente en formación profesional

empezó bastante antes la formación profesional empezó antes y realmente los primeros programas establecidos entre el año dos mil ocho y dos mil once fueron ikasi eta lan y luego a partir del dos mil doce el programa hezibi respecto a los datos no voy a hacer el recorrido porque no los tengo aquí pero sí le puedo decir que el incremento del dos mil quince dos mil dieciséis al dos mil dieciséis dos mil diecisiete en cuanto a alumnos ha sido de un ochenta por ciento es decir pasando de setecientos cincuenta y nueve a mil doscientos setenta y en el número de empresa

realmente es importante el trabajo que se está haciendo la implicación y realmente la apuesta que hacemos todos porque como usted ha dicho y también lo ha dicho el lehendakari sobre todo es que nosotros hacemos una apuesta por el empleo

las empresas que usted dice también tenemos que tener en cuenta el sector de empresas que tenemos principalmente pymes por lo tanto sabemos también lo que cuesta en esta comunidad el hecho de que las propias empresas se involucren y realmente están muy involucradas y lo están haciendo en cuando a la financiación vale de acuerdo usted me ha dicho nosotros

los criterios los acordamos con las empresas los sindicatos y los centros en el consejo vasco de formación profesional es decir no son unos datos que nosotros nos inventamos

están ahí acordados la financiación pública en base a esos criterios está en el departamento y la financiación de los centros concertados tiene que salir mediante orden con unos criterios ahí aprobados también y luego además está la financiación

helburuarekin eta jarrerarekin azalduko naiz batetik azaldu zenuen literalki para el periodo dos mil diecisiete dos mil veinte

intención es que el setenta y cinco por ciento de la ciudadanía menor de veinte años sea bilingüe ez dugu zalantzarik jatorrizko euskaldun guzti guztiak

señor arzuaga el cumplimiento de la ley una vez que la ley se aprueba el cumplimiento

ni a las policías locales les corresponde realizar ninguna valoración política de la ley lo que les corresponde es tratar de evitar que se cometan infracciones penales

y si procede por supuesto que se sancionen en definitiva que se cumpla la ley para garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales y libertades públicas en función de lo que establece la ley mire el cincuenta y cuatro por ciento de los expedientes incoados en dos mil dieciséis

policías locales lo fue por infracciones de consumo o tráfico de drogas o por tenencia ilícita de armas el cincuenta y cuatro por ciento drogas y armas

se correspondió con desórdenes graves daños deslucimiento de bienes

o abandono de animales incumplimiento de restricciones de circulación y el cuarenta por ciento restante

dos mil ciento ochenta y dos expedientes incoados recogen faltas de

resistencia a la autoridad concentraciones no comunicadas y ocupación de inmuebles o vía pública si nos atenemos a ese cuarenta por ciento que considero que es el que

su pregunta estamos hablando de un expediente por cada

de dos coma cinco expedientes incoados por cada

a la vista de los datos creo sinceramente que

respuesta profesional y ajustado a la realidad en la aplicación de la ley de protección ciudadana eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia

no es una cuestión de poco o mucho es una cuestión de que este parlamento dijo nada y

que vulnera derechos fundamentales y le voy a ofrecer un derecho vulnera toda la ley mordaza en su completitud y es el derecho a un juicio justo y con todas las garantías ahí tiene un derecho que la ley mordaza agrede

estuvo aquí juan calparcasolo fiscal general

y mostró su preocupación por las conductas que antes eran infracciones penales con la ley en la mano infracciones penales

las garantías de defensa siempre son menores y dibujaba un panorama en el cual había más sanciones más graves

con menos garantías siempre han existido los hechos siempre ha existido la casuística antes estaba lo que era irrelevante y estaba por otra parte lo que era relevante para ser llevado a la atención de un juez que investigaba decidía con todas las garantías ahora se amplía la brecha existente entre lo que era irrelevante y lo que era relevante penalmente para ser sancionado administrativamente en este caso por un policía concretamente por el

usted va a echar balones fuera y va a decir que también las policías locales están

encontrado algunos casos pocos pero es cierto igualmente que es la ertzaintza quien acoge estos expedientes quienes los tramitan y al final para que la resolución la acabe dando el señor gervasio gabirondo a quien corresponde la responsabilidad de ello

de que no aplicará la ley mordaza porque el señor gabirondo es parte y al mismo tiempo es juez es parte porque él acoge la palabra de un subordinado policial para el cual es ley lo que va a decir y es juez pero es un juez sin garantías ante el que no cabe alegación ante el que no cabe contradicción y ante el que no cabe defensa y que va a adoptar una decisión que vulnera derechos

el derecho a que una persona pueda tener un juicio justo y se pueda defender con todas las garantías esta brecha entre lo que era

puede ser así y por eso usted ha aplicado esta ley cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho veces o puede ser así que es lo que

al respecto sancionando discrecionalmente a la ciudadanía vasca no es como va usted a conseguir una policía de proximidad

en que hay que cambiar algunas partes de esta ley pero si considera que hay que cambiarla

el partido nacionalista vasco ya el veinte de enero presentó una proposición de ley de reforma de la ley orgánica de protección de seguridad ciudadana

sinceramente le decía antes creo que las policías locales y la ertzaintza tienen un criterio de respuesta profesional a la aplicación de esta ley en cualquier caso insisto una proposición no de ley con criterio político para que una ley no se cumpla

el incumplimiento de la ley por parte de quienes tienen que hacerla cumplir y por quienes tienen que aplicarla insisto

en aplicación del régimen sancionador un dieciocho coma dos por ciento tienen su origen en acta denuncia procedente de cuerpos de policía local es decir el mayor todas las localidades lo están aplicando

de la ley se derivaban por vía judicial ahora se tramitan en vía administrativa pero insisto si no están de acuerdo con la ley pongámonos manos

me gustaría que me diga usted si algún cargo de

en algún momento ha incumplido alguna de las leyes porque que yo

de banderas españolas las veo colocadas las he visto cómo han colocado
en diputaciones y ayuntamientos eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia

bi urte baino gehiago daramatenak eskolara joan gabe considerando que los niños son los más vulnerables en este contexto especialmente los que emprenden el viaje solos

estos niños están en riesgo de sufrir abusos caer en manos de traficantes y redes de trata y desaparecer del radar la erradicación

es la única opción que tienen aquellos niños que no tienen familiares en otros países europeos y por lo tanto no pueden optar a la reunificación familiar

solo novecientos refugiados han llegado a españa a través de la reubicación y el

las comunidades autónomas también tienen el poder y la responsabilidad moral

plazos para la acogida de los menores no acompañados ondorioz eusko legebiltzarrak